parlamentarias y parlamentarios esta moción trae causa de la interpelación que se le hizo a la consejera sobre el exceso de ruido en los comedores escolares

que hicimos los grupos parlamentarios a distintos colegios

la realidad de lo que planteaban las asociaciones que el ruido en los comedores es creo que no exagero si digo difícilmente soportable

lo dije en la interpelación no estamos hablando de escuela concertada y escuela pública no estamos hablando de trilingüismo no estamos hablando de ninguno de esos temas estamos hablando de algo que es de sentido común y

prácticamente tuviera los mismos datos que nosotros porque hay ocasiones en que

la oposición un grupo de la oposición trae unos datos y el gobierno trae otros y siempre queda la duda

de qué se habrá consultado de quién tendrá razón de qué lectura se hace

que aportó la consejera y ese es un punto de partida en común que es

y voy a recordar los datos decibelios recomendados en los colegios cuarenta decibelios en las normativas la

provocan daños a la salud y el último dato que también lo compartíamos con la consejera que no viene tanto de las mediciones

ochenta ochenta y cinco decibelios con picos de cien y lo recuerdo más de cincuenta y cinco decibelios

entonces parece que partimos de una postura en común vamos a ver ahora con que no estamos de acuerdo con lo que nos explicó la consejera la consejera

había dos vectores dos vectores claros por una parte eran los espacios físicos y por otra parte la conducta social

ahí estamos de acuerdo pero dijo que los espacios físicos se atendían a petición de los colegios es decir era una postura reactiva no proactiva

pero si nadie se queja aquí no se mueve nada no nos parece correcto la responsabilidad de esos edificios es de la consejería de educación más que la adecuación a la normativa de esos edificios es de la consejería de educación

aunque nadie se queje hay que ponerse solución ese es el primer aspecto

y otro que surgió en la comisión de educación que hemos tenido esta misma semana es que la consejera de acuerdo desde luego con nuestro planteamiento y además diciendo que probablemente a veces además parece una carrera de quien es más listo y quien se ha dado cuenta antes

pero lo referían al próximo plan de infraestructuras y nosotros no estamos de acuerdo por una razón porque insonorizar un espacio

no hay más que entrar en google y ver que hay multitud de empresas con multitud de recomendaciones

en multitud de espacios muy similares que ofrecen paneles que

el sonido y me van a permitir que sea tan

pero es que en las explicaciones de cómo se ponen algunos se ponían con adhesivo de doble cara porque no pesan

entonces estamos hablando de una obra menor no estamos hablando de una obra mayor

lo vamos a llevar al próximo plan de infraestructuras si hay que pintar algo si hay que arreglar una calefacción

eso no tiene lugar en un plan de infraestructuras es por eso que nosotros hemos presentado

en la que pedimos primero que se insonorice que se haga un plan de medición un plan general de medición de los espacios de los decibelios

para remediar las situaciones distintos grupos han intervenido añadiendo su punto de vista y la verdad es que creo que

no todo el mundo está de acuerdo en todo pero por ejemplo quiero decir que

que aunque en una versión muy simplificada lo haya aceptado es

el estudio del ratio que no es un compromiso más que para estudiar el ratio de los que colaboran en cuidar los cuidadores de los comedores escolares por qué porque en ese segundo vector que decía la consejera en la que hablaba y además salió en la prensa diciendo que iba a poner semáforos para que

se necesita la intervención humana y claro

les voy a poner los ejemplos que vimos nosotros en los centros un comedor con noventa niños

que tiene dos turnos y tiene solo dos cuidadoras

y en esos cuarenta y cinco minutos dos cuidadoras deben servir el primer plato a los noventa niños

a los noventa niños servir el segundo plato a los noventa niños retirarlo y

para preparar el segundo turno las personas que van a tener que hacer una labor educadora de pedir tonos más bajos van a tener que ser

los cuidadores o los asistentes de los comedores hagamos un estudio para ver si para conseguir ese segundo vector del problema

que era la educación de los niños pues no estamos muy escasos en el factor humano y el pnv

aceptado y es de agradecer y el resto de los grupos también han mostrado

por lo cual este grupo está muy agradecido y este tema va a salir en muchos puntos por total unanimidad no en todos

hori antza delako una forma sencilla de control del nivel del ruido

dietaren kalitatea eta momentu honetan ere zarataren arazoa el tema de hoy se puede abordar desde distintos

desde un punto de vista educativo desde un punto de vista sanitario y también desde un punto de vista medioambiental pero también desde un punto de vista de condiciones laborales de los y las profesionales del sector porque hablamos del ruido de los comedores y también es cierto que no podemos aspirar de los museos pero creo que algo podemos mejorar

se señala y los usuarios y usuarias de los comedores señalan

y el problema del ruido relacionándolo también con los espacios en los que están los comedores pero ese problema del

de los centros por eso es importante lo que venía en la moción y también mejoras que hemos introducido

desde nuestro grupo también proponíamos el conjunto de las instalaciones porque pensamos que

concretamente de los comedores por eso también introducíamos la aportación del plan integral que se queda un poco

escaso además introducíamos a los puntos en los que

de sensibilización al alumnado pero también al conjunto de la comunidad educativa para mejorar la calidad del ambiente que eso también iba a mejorar por tanto la calidad

que como decía votaremos por puntos porque se ha quedado un poco escasa también introducíamos mejoras en la moción en ese plan integral de lucha contra

que utiliza las instalaciones la calidad de las mismas tanto como las obras menores como comentaba la señora bengoechea como en otro tipo de intervenciones mayores que haya

o las normas o los pactos de convivencia que dentro de los colegios

se llegan también desde un punto de vista de lo que estamos hablando es de la gestión del ruido la desaparición del ruido probablemente es completamente

mejorando la gestión del ruido en los centros escolares pues yo creo que se mejorará y nosotros y nosotras creemos que se mejoraría la calidad educativa los problemas también que hay

importante la generación de entornos amables por ejemplo para mejorar la audición o para evitar problemas también para el alumnado con necesidades de apoyo educativo especial un entorno mejor más

al final también ayuda a mejorar

introducíamos también el tema del plan de infraestructuras y también nos parecía importante y muy positiva una de las medidas que introducía en este caso el grupo de eh bildu sobre el tema de la mejora de los

en esa propuesta de transacción porque como decía al principio el tema que se puede coger o de forma aislada o de forma integral pues como decía al principio es un componente educativa sanitario medioambiental pues también es fundamentalmente de las condiciones laborales del personal

los problemas y las movilizaciones que ha habido recientemente y que esa mejora de los ratios que además sin meternos en lo que son los acuerdos

otra infinidad de puntos tanto en el departamento de educación como en otros tantos es mandar un guiño a que en esas negociaciones se ratio entre el personal y la cantidad de alumnado

una mejora de ello contribuiría por tanto a mejorar la calidad a mejorar también la gestión de los conflictos que hay entre el alumnado como los ejemplos que he comentaba la señora arroyabe por eso hay elementos en los que estamos de acuerdo y otras

gracias presidenta bien yo voy a ser breve porque este

y por lo tanto los temas de sentido común no debieran de suscitar

en este caso sí como bien decía la señora bengoechea la organización mundial de la salud

partiendo que a partir de los cincuenta y cinco decibelios afecta a la salud

por el que se desarrolla la ley de diecisiete de noviembre del ruido en lo referente a zonacificación acústica

decibelios el nivel recomendando en los comedores escolares

nos compete crear y asegurar escenarios y lugares en los centros escolares que agrupen estos comedores para alumnos y alumnas que sean seguros y que por supuesto no afecten a la salud es cierto que como argumento usó un ejemplo que no compete estrictamente a euskadi no compete porque se hablaba de cataluña en concreto y no se han hecho sonometrías en los comedores de los colegios de esa autonomía

y profesores o profesoras y sobre todo en los niños pero ello no implica que no se dé esta situación en los comedores

y los decibelios causados y el ruido que se genera puede sobrepasar el límite establecido por la oms

esta es una situación que afecta alumnos y alumnas que además conviven con ella

y profesoras que también se dificulta se dificulta por tener que enfrentarse a ruidos constantes y les lleva a tener que hacer un mayor esfuerzo para desarrollar su labor

y las alumnas porque el ruido además de afectar a la salud afecta finalmente a la capacidad de concentración y por consiguiente repercutirá también e incluso en los resultados académicos

y está trabajando ya en los entornos donde están ubicados los comedores escolares para la mejora de las condiciones de esta prestación de servicio

también para hacer de este espacio un lugar saludable hay más factores que puedan afectar para la salud y la seguridad de los alumnos que la simple alimentación y este problema es uno de ellos es cierto que a la hora de realizar esas mejoras hay que tener en cuenta

pero se debe lograr reducir esa contaminación acústica y hacer las mediciones pertinentes para conocer

y actuar en consecuencia dotándoles de las medidas necesarias para intentar revertir esa situación además el servicio de prevención del departamento de educación está estudiando y analizando esta situación con la colaboración de los colegios

es por ello que se ha presentado esta enmienda con el partido popular partido nacionalista vasco y partido socialista de la que yo me felicito

en los centros escolares en los que sea necesario a fin de poder elaborar un mapa estratégico del ruido para evaluar la contaminación acústica a la que están expuestos los niños y niñas se insta también al departamento a que colabore y presente la comisión de educación un plan de reducción

porque desde luego lo que nos corresponde ante todo es garantizar que los niños y las niñas

lo más saludable posible y hablando de educación porque esto también es educación hay que evitar cualquier problema que pueda generar a los alumnos un mal entorno de aprendizaje que cause

de sus capacidades yo me felicito de verdad por el acuerdo alcanzado porque como decía la representante de bildu los comedores deben ser también un espacio educativo más dentro del colegio y para que lo sea tienen que tener condiciones agradables para profesionales que atienden el comedor para los profesores y también para los niños por lo tanto entendemos que una vez solucionado el aspecto material o edificatorio de los edificios que albergan los locales de comedores queda una parte muy importante que es lo que recogemos en el punto quinto que dice el parlamento vasco insta al departamento de educación a diseñar y poner en marcha una campaña de sensibilización extra en todos los centros educativos que tenga como objeto

y con un nivel de ruido aceptable por una cosa muy sencilla el local puede estar perfectamente adaptado el ruido puede haber desaparecido pero los niños siguen hablando

siguen elevando el tono por lo tanto eso requiere de una labor educativa de aprendizaje y de concienciación de la forma de expresarse de forma amable de forma razonable porque eso también es una parte importante para conseguir

un espacio educativo no solo para la alimentación sino también amable para toda la comunidad educativa muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

y parlamentarios poco queda que decir en realidad lo que sí nos gustaría a nosotros es establecer prioridades

como administración y entiendo

lo que debemos asumir es lo que es responsabilidad nuestra y la primera responsabilidad nuestra son los espacios físicos nos decía la representante del partido nacionalista vasco que puede ser que en algunos colegios o en unas escuelas no haga falta yo me pongo a pensar

muy muy muy antiguos que quedan pero los que se han hecho de los años desde los principios de los ochenta hasta aquí

suelo de terrazo paredes de bloque y cubierta de vigas de cemento y eso se repite

mayoría de los centros hay algunos antiguos que se han remodelado

cerrados y que tienen unas paredes muy gruesas en bilbao todavía se usan algunos edificios que se hicieron en la

y probablemente esos absorben mucho más el ruido y no sé si aquí

pero no sé si en vitoria habrá todavía colegios de aquella época de la

pero la mayoría de los colegios hechos de principios de los ochenta a aquí

higiénicas probablemente y por razones de fácil mantenimiento tienen esa composición entonces en esos el ruido el ruido rebota entonces para nosotros por eso lo principal

arreglar el espacio físico porque eso sí que es nuestra responsabilidad y no con gran coste ya les digo hay empresas multitud que se dedican a esto

que es no es muy difícil ponerle

un buen remedio volviendo a los niños cuando visitamos ese centro tuvimos como interlocutores al grupo

representaban no quiero exagerar pero creo que tengo en la cabeza la cifra de once centros de los alrededores y a mí me impresionó que estos representantes de once centros

es que no reconocían a los niños en el comedor por el mal comportamiento que tenían que no se repetía en otras áreas

de la vida de ocio ese mal comportamiento ellas lo achacaban a la irritabilidad y a la excitabilidad

los altos decibelios eso me acuerdo muy bien

pastor quiero decirle que sí es verdad hemos usado el ejemplo de cataluña pero ese también lo ha usado la consejera

porque aquí no hay datos entonces es un dato que nosotros utilizamos porque es la comunidad autónoma que ha realizado las sonometrías pero nos agradó ver que son los mismos datos que estaba manejando la consejera

para nosotros primera prioridad los espacios físicos y a partir de ahí la siguiente prioridad es el área educativa la sociabilización tranquila

yo desde luego no ridiculizo ni los semáforos que los usan en muchísimos sitios ni otras cosas que propuso la consejera

como son la vajilla de policarbonato los vasos también de lo mismo los tenedores

reconozco la aportación de eh bildu porque en esa nueva sociabilización en el comedor vamos a necesitar recursos humanos los niños

por muchos semáforos que les pongan y por mucho que el ruido no rebote necesitan recursos humanos para mejorar y yo en los segundos que me quedan aprovecharía para introducir un tema que sé que

pero que es el tema del voluntariado quizá debiéramos estudiar si esos recursos humanos pudieran venir del voluntariado muchas gracias

yo no lo ridiculizo nos dijeron allí en cuanto pasa de moda nadie les hace ni caso entonces vamos a ver

decía la señora de bengoechea a la que le tengo que agradecer efectivamente que asuma

que el tema de los ratios no son ratios son personas es tan sencillo o sea no hablamos de semáforos hablamos de suavizar los jantokis de hacerlos más amables lo hemos dicho y lo repetiremos una vez más

entonces vamos a adecuar las condiciones vamos a hacer un espacio educativo un lugar amable no sé si me gusta mucho la palabra pero un lugar cómodo para estar no se pide tanto

donde se pueda comer alimentos sanos y ricos y aquí sí que entra también lo que vimos en muskiz en muskiz no fuimos porque nos dio una varita en la cabeza fuimos porque había problemas

es un tema que se debe trabajar desde distintos aspectos lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir como sabemos poner semáforos puede servir el primer día en el momento que hace gracia hasta que pasa la gracia

hay que pensar en las personas no solamente los niños y niñas que llegan ahí en un momento de desahogo sino en las personas que les están cuidando decía el señor pastor

el tráfico de una ciudad entre cuarenta y sesenta entre el tráfico de una ciudad y un motor de escape quién de esta cámara iría a comer mañana a un comedor pagando un menú bastante caro

el debate está en la sociedad este gobierno va por detrás vamos subiéndonos al carro la situación de los jantokis es mala no solamente en ruido sino en la comida en las calidades en todas sus condiciones en los ratios efectivamente en todo yo

mis hijos puedan ir a comer a casa y como yo el noventa por ciento de las personas que tengan posibilidad de que sus hijos coman en casa que esa es otra el ruido

solo es un síntoma de este sistema nada más es tratar un espacio pedagógico como si fuese una simple cafetería a la que tienes que ir obligatoriamente a comer yo creo que una vuelta sí que se merece y ya

las enmiendas y la erdibidekoa que hemos presentado que ha salido

señora bengoechea a mí me preocuparía que el gobierno le felicite por la que presenta pues significa que

bueno a mí me parece que la iniciativa de hoy queda conformista queda de manera un poco resignada queda un poco a más de lo mismo y voy a poner una palabra queda un poco acomodaticia o sea nos acomodamos ahí porque seguimos sin tomar medidas viendo si vamos a seguir trabajando al pnv y al psoe absolutamente felicitarles porque consiguen aprobar una cosa que no marca nada no marca grandes objetivos que sí que pone un carril pero es que debería estar hecho o sea que por eso lado

ikusten ditugu primero fue la negación luego el ataque

las supuestas irregularidades y ahora es la defensiva un sí pero no azkenean ikerketa txosten bat enkargatzera behartua

geratzea el gobierno dice que es el primer interesado en investigar y esclarecer lo sucedido espero dugu hala izatea eta ez geratzea tramite burokratiko batean dice que está dispuesto a repetir los exámenes

hau da hemen muinean dagoena no queremos dudar de la palabra del consejero pero entonces por qué no ha tomado la iniciativa desde el primer momento

no por nosotras ni por los grupos de la oposición sino por respeto hacia las personas opositoras por respeto y con humildad

intentando ocultar la realidad a la opinión pública y hemos visto un director de recursos humanos que ensalza las garantías del proceso

pasas por el aro sí o sí para conseguir plaza fija hori da dagoen sistema ez da kasualitatea kontratu eredu desberdinak egotea osakidetzan eta

un simulacro de ope se podrá hacer una ope de cartón piedra

y a correr gurea ez

lo que más me sorprendió al pasar de atención primaria a la atención especializada hospitalaria

para cubrir las plazas vacantes de médicos especialistas son habitualmente una pantomima y que esto es un hecho conocido y tolerado o menor medida por compañeros y compañeras la administración

conozco de primera mano el funcionamiento de esta farsa me consta por testimonios de colegas de otras especialidades que en muchas de ellas la dinámica es similar los tribunales calificadores para el proceso selectivo

están compuestos en una gran proporción por jefes y jefas de servicio ellos se reparten las plazas a adjudicar y en base a su listado los elegidos o elegidas les entregan antes de la prueba preguntas

o todo el examen a las personas aspirantes a los que les toque tener plaza en esa ope la identidad de la persona examinada en cuenta también a la hora de corregir la prueba este método tendría la bondad teórica de ir adjudicando las plazas según la antigüedad de los aspirantes pero como es fácilmente imaginable no es el único criterio que se sigue a la hora de otorgar una plaza es difícil que a alguien díscolo se le dé la oportunidad

se saltan la cola a qué conduce esto que para muchas personas trabajadoras hospitalarias es un secreto a voces a formas de administración amiguismo intrigas de palacio en definitiva a la triste estampa de servidores y servidoras públicos y públicas gestionando recursos y sueldos públicos como propios como usuaria de la sanidad pública me resulta abochornante pensar que muchos de los y las médicos que mantienen un hospital

con independencia de su competencia profesional la han podido obtener haciendo trampa en un examen para terminar quiero hacer desde aquí un llamamiento a las

sin miedo esto se tiene que acabar las manos que nos dan de comer son las de la ciudadanía vasca no la de nuestros y nuestras superiores a las y los que se sienten a gusto chapoteando en este fangal me gustaría recordarles que encubrir o participar

es corrupción aunque lo disfracemos de folklore o creamos ciegamente en su inevitabilidad compañeros y compañeras si sabéis que el emperador

es hora de que deje de hacer el ridículo y se vista una vez cierro comillas este es el extracto de una carta

en elkarrekin podemos pensamos que no podíamos permitir que esto estuviese pasando

mi grupo contactó con una serie de afectados y afectadas por estas prácticas dispuestos a colaborar para poder poner fin a este tipo de corruptelas

el primero ararteko le sugirió que en el momento en que ocurriera la filtración que denunciaban planteasen el asunto ante la administración para que

y si esta no le contestaba podría de nuevo presentar su queja ante dicha institución la fiscalía

pre procesales al carecer los hechos de relevancia penal alguna ninguno de los afectados ni afectadas presentó reclamación previa en osakidetza a represalias elkarrekin podemos consideró que la única forma de convertir una sospecha en prueba era registrar ante notario un acta de manifestaciones donde se indicaban los nombres de las personas que nos aseguraban iban a ser adjudicatarias de las plazas por haber recibido el sobre en cuestión

al comprobar que efectivamente las plazas estaban adjudicadas a priori habíamos acertado al pleno

y segunda prueba siguiendo el mismo patrón en otras tantas pruebas de especialidad y de las que ya pedimos su paralización y hoy de nuevo nos ratificamos en ello

únicamente ha abierto expediente administrativo y paralizado cuatro especialidades por qué cuatro y no catorce

nosotros lo tenemos claro no sospechamos sobre todos los exámenes de hecho creemos que hay que respetar a los más de mil miembros de los distintos tribunales de la ope dos mil dieciocho

que en este momento ya se han examinado o están en proceso de ello el pasado fin de semana comprobamos que las ope celebradas transcurrieron con total normalidad

ninguna obtuvo un cien algo dentro de la normalidad el señor darpón rebajaba el alcance del fraude de la ope a un solo

unas declaraciones que evidencian con qué normalidad se aceptan este tipo de irregularidades el porcentaje

cero por ciento a todas las personas opositoras a todas se les debía haber garantizado la igualdad de oportunidades no solo al noventa y siete coma cinco por ciento tenemos un consejero que actuó tarde y mal y que no confía en la estadística pero contrata un estudio estadístico y psicométrico para resolver esta encrucijada

elkarrekin podemos exige una investigación independiente exhaustiva e imparcial de todas y cada una de las ope de especialista

como es la igualdad de oportunidades y exigimos depurar responsabilidades exigimos medidas que garanticen que los procesos de selección sean

garantía de igualdad de oportunidades para las personas aspirantes porque creemos que hay que cuidar a los y las profesionales de osakidetza

no es filtrarles el examen eso se llama corrupción clientelar en elkarrekin podemos queremos que nuestro sistema público de salud sea un referente estatal e internacional en su resultados y productos ahora tenemos una oportunidad si el señor darpón toma las decisiones correctas para limpiar la ope dos mil dieciocho

demuestren que existe voluntad inequívoca para acabar con este atropello a las bases de la ética profesional y que promueve favoritismos vistan por favor al emperador mila esker

galderak bideratu genizkion gobernuari yo espero señor consejero que hoy no se enfade tanto como el pasado día ocho cuando

los grupos que representamos la oposición en este parlamento

de la actuación del gobierno del consejero y también de la directora general de osakidetza me estaba dirigiendo al señor arriola pensaba que era el señor darpón

a mi izquierda más a la derecha del señor arriola pero no está

pero como decía los acontecimientos han ido sucediendo y nosotros consideramos sinceramente que tanto

y digo esto porque reaccionaron tarde y mal a nuestro entender y sobre todo también a tenor también de unas declaraciones de este fin de semana creemos que han minimizado las posibles o las irregularidades las sospechas o indicios en relación a las irregularidades que han podido haber en

y digo esto porque el lunes la primera comparecencia fue el lunes a las dieciséis cero de la tarde después de que los grupos de la oposición

y entonces el señor consejero cuando sale el lunes dice que no hay denuncias y que no se van a paralizar ninguna

especialidades médicas hospitalarias dos días después no el consejero el miércoles día seis sale la directora general de osakidetza en una comparecencia pública acompañada por el director de asistencia sanitaria

y habla ya de denuncias el consejero sigue sin dar explicaciones y el consejero

todas las consecuencias y las informaciones que se estaban conociendo en relación a los indicios de irregularidades de esta ope aparece aquí el viernes en este parlamento

inadecuado en relación a las críticas que legítimamente hicimos los grupos de la oposición y una vez más el señor consejero

circunstancias por qué digo esto porque no se puede echar balones fuera y no se puede echar balones fuera cuando ya

hospitalaria paralizada médica hospitalaria paralizada cuando el consejero aparece aquí el viernes

con más pruebas suspendidas cuando el ararteko ha iniciado una investigación de oficio

se han trasladado denuncias y por lo tanto va a proceder

diligencias de investigación correspondientes cuando se han abierto expedientes informativos en el ámbito de osakidetza que también nos gustaría saber quien está elaborando esos expedientes cómo se están elaborando pero bueno toda esta información tenemos ocasión de

por lo tanto por una parte no se ha estado a la altura de las circunstancias

y otra cuestión que a nosotros nos ha parecido grave y que no ha dado tranquilidad es dar las suficientes garantías a todos los opositores

que aspiran a tener una oportunidad de futuro a tener un empleo estable

que se han convocado también quiero recordar que esta ope empezó mal y esta ope empezó mal porque a nuestro entender

creemos y así lo consideramos y a tenor de las informaciones que tenemos y por eso también hemos pedido información exhaustiva en el parlamento

el procedimiento no ha sido acompañado de las debidas garantías que tenían que dar cobertura a todo el procedimiento y me estoy refiriendo a los

la elaboración de las pruebas el grado de dificultad de las pruebas a quién se ha contratado mejor dicho a quién ha contratado el ivap para la realización de las pruebas esos expertos que ya sabemos que han firmado y nos reiteró el consejero una cláusula de confidencialidad pero

confidencialidad y quienes han hecho esas pruebas de los exámenes por encargo del ivap es decir también qué pasa con las sospechas

de los exámenes si hay sospechas y filtraciones

en qué cadena de todo el procedimiento se han producido y esto

no es sembrar una duda generalizada pero por eso creemos precisamente para no sembrar una duda generalizada y precisamente también para poner en valor

actuar con absoluta contundencia y llegar hasta el final y hay una serie de cuestiones que creemos desde el grupo popular que tienen que quedar absolutamente esclarecidas en estas fases de investigación cómo se han hecho los exámenes quién ha hecho los exámenes cuál ha sido el grado de dificultad de los exámenes la adecuación de las pruebas realizadas

la coincidencia del número de aprobados con el número de plazas ofertadas que parece que hay en algunas categorías y que ha levantado sospechas

se han podido producir esas posibles filtraciones yo voy acabando tengo que decir que hemos llegado a un acuerdo de transacción entre los tres grupos de la oposición

yo creo que había muchos puntos en común para llegar a un acuerdo pero también ha habido

trabajarlo y en lo que respecta al partido popular bueno nosotros estamos satisfechos por el resultado del acuerdo final pero sobre todo porque aparecen puntos que nosotros hemos introducido en nuestro texto

que creemos que tenían que recogerse de todas formas

llegar hasta el final llegar hasta el final si queremos además

y que no se ponga en duda la labor de tantos profesionales y la profesionalidad

depurar responsabilidades y llegar hasta donde haya que llegar y cualquier irregularidad también

no que sea aquí el gobierno fruto de las investigaciones que está realizando y los expedientes e informaciones que dictamine y que concluya

la fiscalía proceda a abrir las diligencias informativas que considera

nos parece también importante que de cara al futuro se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad vigente nos parece también que de cara a futuro

se garantice de forma absoluta los principios que parece

a tenor de las sospechas existentes no se han garantizado en esta ope

y velar por la absoluta transparencia e imparcialidad en un proceso selectivo de estas características

que el gobierno nos remita un estudio en el plazo de cuatro meses con propuestas y con aquellas medidas que sean necesarias a tenor de las conclusiones de las investigaciones que resulten

de todas las irregularidades que se hayan podido detectar y que se arbitren medidas para garantizar que las ope en un futuro se ciñan

no nos parece tampoco mal y así lo hemos apoyado que se pueda crear un grupo de trabajo para que analice los procesos de selección de las ope y también que pueda

es que se analicen los procesos de selección de las ofertas públicas de empleo

y que obviamente están bajo sospecha que se subsanen absolutamente

que tiene que ser así en cualquier proceso selectivo y en cualquier oferta pública

que sea convocada por este gobierno nada más muchas gracias eskerrik asko garrido

gracias presidenta y bueno días a todos después de haber escuchado a los tres grupos de la oposición creo que

la preocupación por la limpieza del proceso de este y de todos la preocupación porque el procedimiento sea limpio en esta oposición y desde luego en todas las que convoque el gobierno vasco

su trabajo de la mejor forma posible por tanto creo que

pero finalmente parece que no hemos podido concluir en compartir la enmienda transaccional en todos los puntos después de unas semanas de polémica mediática de preguntas e interpelaciones en el parlamento y de intervenciones sobre todo

por fin hoy debatimos dos mociones relativas a la exigencia de esclarecimiento de lo sucedido

pactado con los sindicatos que así lo han querido porque fue pactado culmine de forma limpia y con todas las garantías es lo que merecen las decenas de miles de personas que llevan tiempo buscando una oportunidad de empleo estable y de calidad para prestar un servicio público y esto es lo que merece también la totalidad de la ciudadanía vasca que es la que debe recibir este servicio que sus profesionales han accedido a su puesto demostrando que son los más capacitados

después de contrastar la información a la que creo que todos hemos tenido acceso y trabajarla de una forma rigurosa con las informaciones recibidas creo que puedo comenzar afirmando

se realiza introduciendo mejoras pactadas y demandadas por una parte de la representación sindical se realiza de una forma transparente y profesional y esta ope

es cierto que una parte de los sindicatos consideraban y consideran también a día de hoy insuficientes el número de plazas pero ahí quedaba la falta de acuerdo

todos conocemos la cronología de estas oposiciones el día uno de junio conocemos todos el primer indicio

actúa con rapidez porque lo hace ese mismo día por tanto no podemos estar de acuerdo en decir que no se actúa con celeridad y ya se han tomado las primeras decisiones

se ha encargado un análisis a la universidad de oviedo que también se ha dicho así un análisis independiente de todos los resultados para ahondar en la transparencia y en las garantías por otra parte se han paralizado cautelarmente y se han abierto expedientes informativos en cuatro especialidades y también es cierto que el resto de la ope sigue su curso con normalidad

en esta ocasión no hay dudas de la actuación del gobierno ayer mismo

celeridad y planteaba lo importante que es esclarecer lo sucedido y para ello se trabaja con transparencia y celeridad lo que hasta este momento pide la oposición he comenzado esta intervención hablando de los cambios introducidos en la ope y para el grupo socialista los cambios han sido importantes por un lado los tribunales son paritarios

y lo que no es menos importante se modificó la puntuación de los ejercicios de la fase oposición además de que en esta ocasión la nota de fase de oposición valdría para la ope bi mila hemezortzi

apartando la parte mediática que entendemos así debiera ser diríamos

es la segunda oferta de empleo más importante en la historia de osakidetza reconocemos que fue una ope cuestionada

los tribunales estuvieron compuestos por profesionales y no por cargos públicos y este creo que es un dato a reseñar

existe una comisión de seguimiento hoy en día entendemos que no hay pruebas concluyentes y yo soy de las que creo en el principio de inocencia

pero creemos que no debemos olvidarnos de este principio los socialistas vascos vamos a avanzar en esta cuestión es imprescindible actuar con toda la contundencia y con el rigor necesario para eliminar la más mínima sombra de duda que pudiera haber sobre cualquiera de las pruebas

pero es que esto ya lo ha hecho el gobierno tras la paralización de estas pruebas si se detecta la más mínima irregularidad

el procedimiento para que esas plazas puedan consolidarse con el personal mejor cualificado con plenas garantías de igualdad en el acceso

si se confirman esas irregularidades cuando se detecte el punto en el que se han producido

o en cualquier otro lugar de la administración pública porque no olvidemos que esta ope de estas semanas tendrá continuidad el año que viene y debemos ser extraordinariamente garantistas

podemos hablar de la gestión yo admito que cualquiera sin excepción

creemos que el consejero debe darlas hasta donde conozca porque es su obligación asegurar la transparencia y legalidad del proceso y rendir cuentas en el parlamento

evadir la extensión de las sospechas sobre la totalidad de las pruebas haber llegado a pedir que las decenas de miles de ciudadanos que se han venido currando estas pruebas no se examinen hablar de un clientelismo conocido desde siempre que lo que hace es cuestionar a las más de treinta mil personas que prestan sus servicios en la sanidad pública vasca

y estar en fase algunos incluso de pedir dimisiones políticas sin tener en cuenta las pretensiones de inocencia ninguna objeción a que todo el mundo entienda que debe pedir

de irregularidades o de sospecha para que pudiera haberlas y tengo que decir en esto

hoy que lo estamos haciendo hoy es una pena que no hayamos podido llegar a un acuerdo porque viendo el texto firmado por los tres grupos de la oposición creo que hay más puntos en los que estamos de acuerdo que los que estamos en contra primera intervención solo hablare de una cosa que se ha dicho aquí y que desde luego no puedo pasar por alto porque creo que no es cierto es verdad que el último punto

de que el parlamento vasco en el primer trimestre del dos mil diecinueve creará un grupo de trabajo para analizar el modelo de la política de personal y los procesos de selección en osakidetza y en su caso

los grupos de la oposición saben perfectamente que el gobierno estaba dispuesto a firmar un texto que decía algo tan parecido como el parlamento vasco insta al departamento de salud

mismo plazo forme con los grupos parlamentarios los mismos participantes un grupo de trabajo llamémosle ponencia o grupo de trabajo para analizar el modelo de la política de personal

que sean necesarias en el mismo por tanto creo que efectivamente quiero acabar como he empezado compartimos todos la preocupación de lo sucedido creo que empezando

de esta humilde portavoz parlamentaria que dice que efectivamente lo que ha sucedido en las oposiciones de osakidetza es un escándalo

presentarse a esta oposición pero somos responsables políticos que también debemos trabajar por blindar el nombre y la profesionalidad de osakidetza como sistema

en el resto de españa y en otros sitios pongamos en tela de juicio todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años se venía demandando por parte de los sindicatos la necesidad de cubrir plazas que estaban vacantes porque llegan las jubilaciones y esto hay que cubrirlo

y hoy estamos ante un problema en el que creo que los grupos parlamentarios hoy en este parlamento debiéramos de mirar más porque significa que hubiéramos sido capaces de llegar a un acuerdo en aras a defender el sistema público

por encima de salvar o no al gobierno porque creo que en tela de juicio hoy no está salvar

osakidetza que al final es el quien da el servicio a los ciudadanos y en los que por cierto también estamos incluidos nosotros

de que esta ope se ha organizado de forma transparente y con todas las garantías

muy amplia y muy compleja y que se pueden cometer fallos y errores como en cualquier procedimiento de estas características pero

ante las dudas que se han generado en las últimas semanas es que por parte del departamento de salud y los responsables

para esclarecer todo lo ocurrido con absoluta transparencia y rigor eso es lo que principalmente le pedimos al departamento y al consejero lehenengo

le pedimos que actúe como lo ha hecho hasta ahora con transparencia rigor celeridad y con todas las garantías para esclarecer cuanto antes las dudas que puedan existir en estos momentos porque lo cierto es que a pesar de que hasta el momento no hay pruebas concluyentes

de aprobar pruebas concluyentes ante los primeros indicios de irregularidades ya se optó por adoptar las medidas oportunas ante los hechos que se iban sucediendo y el primer indicio señora garrido se produjo el día uno de junio cuando

con transparencia e inmediatez ese mismo día y al día siguiente el día dos de junio la directora general de osakidetza ya compareció ante los medios de comunicación

en ese momento beraz

entre otros se ha abierto una investigación interna y completa de los ochenta y seis tribunales se ha encargado un análisis independiente a un experto

todas las pruebas los resultados de todas las pruebas se han paralizado cautelarmente

se están analizando a fondo otras ocho especialidades y en el resto de las pruebas se mantienen con normalidad precisamente porque la situación es de normalidad

que ya participa en los expedientes internos de osakidetza y en su caso también a la fiscalía

y el propio consejero de salud comparecerá por iniciativa propia

que el parlamento vasco insta al gobierno a velar por el cumplimiento de la legalidad vigente en las futuras ope de osakidetza norbaitek azaldu diezagula

señora rojo el gobierno no ha contado con elkarrekin podemos para ningún tipo de negociación ha sido durante la señal acústica cuando se me ha lanzado en la mesa

con nosotros no se ha contado yo no he recibido ninguna propuesta por parte ni de su partido ni del partido nacionalista vasco

con lo cual si no ha existido negociación difícilmente va a llegar a acuerdo

y realmente quien cuestiona toda la ope de dos mil dieciocho

que va a hacer un análisis psicométrico de toda la ope no nosotros nosotros hemos dicho una y otra vez que no sospechamos sobre todos los exámenes decimos además que respetamos a los más de mil miembros de los distintos tribunales de la ope dos mil dieciocho que a los más de ochenta mil personas que se van presentando a esta prueba

yo también me quedé asustada al escuchar que tienen miedo a represalias

hace dos semanas que se pidió la comparecencia del señor darpón la directora general de osakidetza y el director de recursos

pero que comparezca el señor darpón a petición propia pues es interesante

después de dos semanas en la penumbra y opacidad total esperemos que no vuelva a ocurrir esto vemos necesario en nuestra enmienda de transacción manifestar indignación ante los indicios de que el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública haya sido vulnerado

a todas aquellas personas afectadas asimismo entendemos

esclarecer con absoluta transparencia las irregularidades detectadas en la ope de osakidetza

exhaustivo de las garantías del procedimiento selectivo el contenido de las pruebas realizadas y la elaboración de los exámenes por parte del ivap y en especial sobre los profesionales a los que este organismo haya contratado para la redacción de las preguntas

el informe externo de la universidad de oviedo toda la documentación analizada en el proceso de investigación

actuaciones realizadas y todas las conclusiones obtenidas creemos necesario dar traslado también a la fiscalía de cualquier indicio de irregularidad para la apertura de la investigación correspondiente así como depurar las responsabilidades que correspondan de las irregularidades que resulten probadas paralizar todos

médica de especialidad médica que estén bajo sospecha hasta aclarar las presuntas irregularidades y establecer garantías que aseguren

y que se repitan los exámenes en los casos que se requiera todas las listas repito deben ser siempre públicas y no después de dos semanas

exigimos velar por el cumplimiento la legalidad vigente de las futuras

en el plazo de cuatro meses una propuesta con las medidas necesarias para garantizar que el sistema de las ope

cumplimiento de los principios de igualdad mérito y capacidad en el acceso a la función pública y con especial referencia

y a la transparencia además también pedimos que en el primer trimestre del dos mil diecinueve se cree un grupo de trabajo para analizar el modelo de política de personal

y en su caso plantear las modificaciones que sean pertinentes
sabemos que ha habido un cambio de modelo pero no ha sido lo suficiente ya que está demostrado que ha habido fraude mila esker eskerrik asko macazaga

sido capaces de alcanzar un acuerdo en los siguientes términos el tema del esclarecimiento de lo sucedido

el contenido de las pruebas la elaboración de los exámenes y en especial los profesionales a los que este organismo haya contratado para la redacción de las preguntas

esto es una petición que planteaba el partido popular en su enmienda en el mes de julio se presenta en el parlamento dicho informe

que ha sido analizada las actuaciones realizadas y las conclusiones

me parece que ante cualquier indicio de irregularidad que no sea

la que haga o dictamine

ante cualquier indicio de irregularidad que se traslade a la fiscalía para la investigación correspondiente y la fiscalía cuando habrá las diligencias

ya verá que hay que no hay si sigue con la investigación o no sigue con la investigación pero nos parece importante que esto quede aclarado o sea que osakidetza ante cualquier supuesta irregularidad

a la fiscalía cuando hablamos de paralizar los procedimientos selectivos de las especialidades medicas bajo sospecha y es que esto se ha hecho no estamos pidiendo nada nuevo

ha tenido sospechas de irregularidades en algunas especialidades médicas hospitalarias se ha procedido a paralizar esas pruebas

y han sido tres posteriormente y la semana pasada conocimos

que otras especialidades están bajo sospecha pues si fruto de las investigaciones

se dan esas sospechas de posibles irregularidades que también se suspendan

esas pruebas por lo tanto creo que nada nuevo sino que obviamente cuando se detecten sospechas de irregularidades se proceda como se ha procedido hasta ahora con el resto de especialidades en las que parece que pueda a ver sospechas

sospechas de que no se han respetado los principios de mérito igualdad y capacidad de oportunidades

es una cuestión que hay que ponerla expresamente en el texto es decir escrupulosamente habrá que arbitrar los mecanismos que sean necesarios para que en un futuro

y sospechas sobre filtración de exámenes o cualquier otro tipo de sospechas en un futuro se arbitren las medidas necesarias para que estas cuestiones no vuelvan

por el buen nombre de los especialistas y por el respeto a una institución que creemos que es respetada por todos los vascos y que la tenemos en gran consideración como es

por lo tanto yo creo que una cosa no quita la otra y por eso nosotros pedimos actuar con contundencia esclarecimiento total

porque yo creo que si algo tiene que haber y cuando uno es responsable de un departamento tiene la responsabilidad de ser consejero o tiene la responsabilidad de ser

lo que tiene que salvaguardar aparte de todas las garantías que rodean a un procedimiento de estas características es que si se han constatado irregularidades y

y poner los medios suficientes para que en el futuro no vuelvan a ocurrir creo que es algo de coherencia y de pura lógica y de sentido común en cuanto al grupo de trabajo pues a nosotros nos parece importante que ese grupo de trabajo

de política de personal vale pues puede hacer hincapié en esa cuestión pero a nosotros y nos parece también muy relevante que ese grupo de trabajo haga hincapié en los procesos de selección de osakidetza y sobre todo teniendo en cuenta que esa no es última oferta pública de empleo que están pensadas

en esos procesos de selección pero siempre dirigidas a garantizar la imparcialidad y la transparencia absoluta

y que impulse también el gobierno vasco nada más muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta primero y como punto previo solicitaría

si no existiera ningún problema y luego señora ubera

que usted y yo hemos tenido le pido todas mis disculpas porque desde luego no era mi intención

y es lo único que he pretendido hacer creo que la relación que usted y yo tenemos no es para contar las conversaciones que tenemos fuera de esta cámara

efectivamente este punto que nacía de una forma más polémica de la que creo que va a resultar en la votación creo que acaba en una ratificación de lo que yo he dicho en mi primera intervención todos estamos preocupados por la transparencia la celeridad y la firmeza todos apostamos por que la investigación se lleve hasta el final para poder concluir de la mejor forma posible

y desde luego creo que todos estamos de acuerdo en que hay que trabajar desde la administración para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse por tanto decir que desde luego el grupo parlamentario socialista apoyará siete de los ochos puntos de los que ustedes han firmado en la enmienda transaccional y el motivo de la no firma o de la totalidad es que

en el último punto en el punto ocho habla de algo que entendemos que no es competencia del parlamento que es una competencia plena del gobierno y entendemos que ahí no debe estar los grupos parlamentarios para

analizar el modelo concluyo esta

podemos seguir subiendo el tono de las intervenciones podemos seguir hablando e intentando incendiar un poco esto pero creo que estamos mucho más de acuerdo de lo que parecía al comienzo de este punto y aunque no hayamos firmado la enmienda transaccional creo que hoy todos

celebrar este acuerdo porque siete de los ocho puntos acabarán siendo votados por la unanimidad de esta cámara nada más muchas gracias

hartzeko en segundo lugar en relación con el planteamiento que hacía la señora macazaga

de lo que usted ha leído del primer turno y lo que ha vuelto a reafirmar es que da a entender como que cualquiera puede deducir que muchos de los especialistas

han podido obtener su plaza haciendo trampas es lo que ha dicho que esto es una pantomima

que es una cosa que se ha hecho a lo largo de todos estos años

desde marzo en mayo ya van al notario registran

es esa aquí los únicos que han venido dopados a este debate es su grupo señora macazaga los únicos que disponen de información que se supone que disponen de una información que el resto no tenemos son ustedes

el principio de contradicción usted ha hablado con las personas a las que acusa de que les han pasado unos sobres en un hotel usted ha hablado con ellos usted sabe qué opinan sobre lo que dice

haga ese tipo de acusaciones eta

gracias señora presidenta buenos días o buenas tardes ya a todas y a todos

dena amaituta no pedimos que no se cumpla la ley ni mucho menos este caso concreto de etb se puede solucionar solamente con buena voluntad y altura de miras eso también porque si se cambia una sola palabra si donde se dice centro de trabajo se pone lugar de trabajo se soluciona el problema los conflictos colectivos de etb se podrían juzgar donde les corresponde que es en los tribunales vascos porque los únicos centros de trabajo de etb están en bilbao

los y las trabajadoras de las corresponsalías eta hori da gaur gure legez besteko proposamenean

señoras y señores del pnv y el partido socialista eso perdónenme eso es un brindis al sol claro que queremos que los conflictos

y que cuando resulte necesario se utilicen medios alternativos a los judiciales claro que sí cómo no y también en los divorcios en las disputas vecinales

antes de llegar a los tribunales pero qué ocurre cuando no hay acuerdo vamos a madrid

y vamos a la audiencia nacional con sindicatos que no tienen representación en etb por ejemplo que no conocen la empresa no hace falta decir tampoco el coste que supondría a las arcas públicas que todos los conflictos se juzguen en madrid el tener que viajar casi

es eso defender el ámbito vasco de relaciones laborales es así como se va a defender al personal de etb barkatu egin iezadazue baina nik ezin dut hori

de la crisis nos aplicaron la reforma laboral nos han dejado sin derecho a la negociación y eso provoca que las trabajadoras y los trabajadores tengan cada vez sueldos más bajos peores condiciones laborales que cada vez más pobres es aquí donde debemos decidir las normas que rigen nuestro día a día eso es el derecho a decidir eso es el nuevo estatus eso es democracia

egun on denoi venimos hoy a tratar

incomprensibles con la dirección o de la dirección de e i te be en su guerra particular con las trabajadoras del ente una más de una

laboral que la dirección no ha querido ni quiere abordar para resolver las justas demandas de la plantilla y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de la misma

hasta ahora hay que recordar que la política de contratación de la dirección de e i te be ha sufrido innumerables reveses judiciales

interpuestos por personas trabajadoras por contratos en fraude de ley un tipo de contrato que se sigue haciendo a día de hoy y que ha tenido un elevado coste miles de euros miles de euros en indemnizaciones y minutas de abogados

de esas multas impuestas por la inspección de trabajo y de la seguridad social es decir un auténtico despilfarro de dinero público como consecuencia de actuaciones que van en contra de los derechos laborales de las personas trabajadoras y del cuidado exigible en el uso de los recursos públicos otro brillante hito en la gestión de la señora

y esto sin que haya asumido ni al parecer vaya a asumir ninguna responsabilidad al respecto una actitud a la que nos tiene más que acostumbradas a todas nosotras

a un acuerdo de transacción demuestra de forma palmaria lo que acabo de señalar y no es otra cosa que la dirección de e i te be que lejos de dar pasos en la solución por medio de su representación sindical perdón lejos de dar pasos a la solución de

así de grave y así de sencillo no se entiende de otra manera en caso contrario bajo qué criterios ha decidido que los conflictos colectivos que afecten al grueso de los trabajadores y las trabajadoras de e i te be en euskadi se vayan a juzgar en la audiencia nacional

nefasta repito gestión de las relaciones laborales y sindicales de e i te be y desde elkarrekin podemos creemos que

de un simple debate técnico procesal esta cuestión viene

de unas decisiones de política laboral cuyo resultado es que la señora

en su ya enturbiada gestión con las personas trabajadoras y sus sindicatos representantes

activo de e i te be no es como estamos comprobando su dirección el principio activo de e i te be como todas sabemos son las personas que día a día trabajan para el ente público

para que el ente público pueda ser un referente de comunicación en nuestro país es gracias a la implicación de las y los trabajadores lo que permite que nuestra ciudadanía pueda acceder a información actualizada de aquello que le afecta

es gracias a esas personas trabajadoras que se levantan de madrugada que tienen horarios intempestivos que encadenan contratos y situaciones de precariedad

de plantilla directa como de aquella externalizada y legalmente en algunos casos como hemos podido comprobar que pese a la precariedad que le impone la dirección de la señora

para que el trabajo este hecho lo mejor posible es gracias a las trabajadoras de los diferentes ámbitos de e i te be que el ente funciona y podría funcionar muchísimo muchísimo mejor si no fuera porque la señora iturbe se dedica a poner palos en la rueda

del principio activo de nuestra radio televisión pública así que es a todas ellas a las que hay que agradecerles el trabajo y dedicación en circunstancias

muchas veces se nos ha dicho o se nos ha hecho el reproche de que nuestras críticas pretenden terminar con e i te be algunas tienen serios problemas para entender

fundada en elementos de juicio objetivos algunas consideran parte de su patrimonio político lo que es patrimonio de todas y de todos y es esta actitud y concepción patrimonial y partidista de lo público lo que está poniendo en serias dudas

es la dirección de e i te be y quienes aún la sostienen la máxima responsable de lo que aquí está sucediendo y conviene que no olvide la señora iturbe que las diferentes ilegalidades que comete como máxima responsable de la gestión

son en definitiva la expresión de una nefasta gestión en lo laboral sin duda y también en otros ámbitos la enmienda que traemos a este pleno plantea que desde la dirección de e i te be se asuma el compromiso de tratar en nuestros tribunales

colectivos que afecten a las personas trabajadoras de e i te be para que se puedan ejercer los derechos legales a través de las representaciones sindicales algo que cualquier dirección

como forma para facilitar en una contraposición de pareceres a nivel

que la parte débil que es la trabajadora no tuviera dificultades añadidas en su defensa por tener que pleitear en tribunales más lejanos teniendo que gastar muchos más recursos también e i te be por cierto o dificultando la intervención sindical en los asuntos

de los grupos que sustentan el gobierno porque de lo contrario se nos mostrará a las claras cuál es el tipo de gestión que promueve este gobierno y esta dirección de e i te be

revanchista y contraria a quienes defienden los derechos laborales en nuestra radio televisión pública vasca eskerrik asko eskerrik asko

debates y preguntas primer debate

que afecta a todas sus delegaciones creo que es el primer debate y un segundo debate sería cómo evitar que cualquier conflicto laboral llegue a

llegue al ámbito judicial yo creo que el primero está perfectamente resuelto a través de un pronunciamiento del tribunal superior de justicia del país vasco firmado por su presidenta garbiñe biurrun en el que en su tercer queda perfectamente claro cuál es el ámbito de actuación el ámbito competencial por tanto entendemos que es un debate que de alguna manera queda

enredando en el mismo y el segundo debate es cómo se puede evitar el primero y sobre todo cómo se puede

termine en el ámbito judicial y nosotros llevamos años

un cambio de posicionamiento de postura de actitud por parte de la dirección de e i te be porque entendemos que los esfuerzos deben de ir encaminados precisamente a lograr acuerdos a través del diálogo a través del consenso a través del acuerdo con la mayoría

termine en el ámbito judicial nosotros llevamos años como decía reclamando una nueva cultura en las relaciones laborales de e i te be

con los tiempos del conflicto y el enfrentamiento que además han generado vamos a decir que grietas entre los trabajadores y trabajadoras del

de los servicios que ofrece el ente público porque ya sabemos que cuando el ambiente entre los trabajadores y trabajadoras es un ambiente que está

no es el mismo eso es evidente y entendemos que hacer las cosas a la fuerza no nos lleva absolutamente a nada y tenemos claros ejemplos en los últimos años se han amortizado plazas sin la mayoría sindical se ha impuesto un ere sin consenso yo creo que finalmente no lleva a ninguna parte este tipo de

por tanto entendemos que no se trata de un brindis al sol como nos decía usted sino de todo lo contrario se trata de aplicar el diálogo y el consenso para resolver este tipo de cuestiones a pesar de que en algunos casos ha habido juicios en los que se ha dado la razón

a la dirección pero entendemos que ese procedimiento no es precisamente el deseable aunque venga amparado por una resolución judicial que ampara las decisiones que ha podido adoptar la dirección por tanto hay que abrir nuevas etapas en e i te be y entendemos que la ponencia que está constituida en ese sentido y además se van a abordar o se están abordando ámbitos muy amplios entre los cuales evidentemente también está esta cuestión como decía tenemos que intentar buscar todos los procedimientos posibles para evitar que los conflictos laborales en e i te be en el ámbito judicial para eso existe el diálogo existe el acuerdo si esto fracasa también existe la alternativa de utilizar

está la mediación que evita que la cuestión termine como último recurso en la justicia que como digo

hay mucho camino por recorrer antes de llegar a esa situación por qué porque se trata siempre siempre siempre de garantizar los derechos

del ente no es una cuestión de servicio público esta sino es una cuestión de preservar y garantizar los derechos laborales de los trabajadores y

que esta sentencia no haya gustado a algunos y algunas pero es que las sentencias no se tratan de dar gusto o el objetivo de una sentencia es no dar gusto a unos o a otros sino de preservar los derechos y garantizar

manera esas sentencias sean conforme a derecho y garanticen esos derechos de los trabajadores y las trabajadoras

dicho esto como decía además de estos dos debates creo que surgen preguntas preguntas del tipo por qué

les parece un escándalo que este proceso judicial se dirima en la audiencia nacional cuando es un conflicto que habla de regularización de trabajadores y

y de barcelona y sin embargo no les pareció escandaloso que se amortizaran puestos de trabajo sin mayoría sindical en ese mismo

regularización que respaldaron es una pregunta que me surge y en esta cuestión creo que cabe aclarar una cuestión que nos parece absolutamente fundamental

centro de trabajo versus lugar de trabajo porque creo o me ha parecido entender que mezclaban ambas cuestiones y son cuestiones muy diferentes el centro de trabajo

es allá donde se desplacen los profesionales y las profesionales a dar o a cubrir la información correspondiente y creo que es un dato

muy en cuenta que un conflicto laboral

impide que sindicatos implantados única y exclusivamente en euskadi y en navarra puedan defender los derechos de esos trabajadores de forma directa o indirecta pues yo entiendo que no nada se lo impide como no les impide participar en un preco

conflictos en este caso creo que pueden defender esos derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras

en euskadi y en navarra porque hay instrumentos hay posibilidades hay herramientas para que puedan estar perfectamente

es lo que les impide personarse en los conflictos que se abran en este caso usted ha generalizado

yo creo que tampoco qué es una cuestión de costes evidentemente el coste es superior si esa cuestión se dirime judicialmente en euskadi o se dirime judicialmente en madrid pero creo que no es en absoluto una excusa y entendemos que los sindicatos y yo estoy

perciben una cantidad económica por parte de las instituciones para que desarrollen su trabajo y también ellos cobran una cuota a sus afiliados y afiliadas precisamente

los gastos o los costes creo que no son una excusa en este caso para impedir

haya donde se dirima el conflicto de forma judicial por tanto se debilitan los derechos de los trabajadores y trabajadoras no

de los derechos laborales de esos trabajadores y trabajadoras no

otras vías para evitar que estas cuestiones terminen en el ámbito judicial sí radicalmente sí cómo abriendo un nuevo tiempo en el cual el diálogo prime sobre la imposición en el que los conflictos mediante la negociación con los trabajadores y trabajadoras a través de los sindicatos y los representados en los consejos de administración correspondientes y como decía no imponiendo manera el criterio único de esa dirección por tanto leyendo su enmienda transaccional entiendo que no hay nada

los derechos de sus trabajadores y sus trabajadoras o de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y de alguna manera no entiendo cómo la dirección de e i te be puede asumir un compromiso para que esos

judiciales se diriman en euskadi cuando entendemos que el ente público no tiene ninguna competencia para poder tomar una decisión al respecto por tanto entiendo que es más una cuestión de decisión judicial

dirección que esos conflictos que terminan en un juzgado y que nosotros entendemos que se deben de evitar llevar a esos juzgados puedan dirimirse en euskadi en otra lugar esa es una cuestión que sin duda es una cuestión

los jueces en este caso y no la dirección de e i te be eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

la he tratado como si fuese una moción consecuente de interpelación porque como usted

ha comentado ha hecho referencia también usted a los efectos de su pregunta para mí son una unidad su pregunta y esta su pregunta en su día al gobierno y esta proposición no de ley

secuencia de acción de control al gobierno y posterior acción de impulso hacia la dirección de e i te be

ese mismo día en el que realiza la pregunta al gobierno sobre la cuestión y la titula

la proposición no de ley sobre la obligación de juzgar los conflictos laborales de e i te be en la audiencia nacional

con el traslado por parte de e i te be de los conflictos colectivos a la audiencia nacional de madrid

amplía el foco de la pregunta hoy también nos ha comentado esto no cuál es la opinión del gobierno sobre que se juzguen algunos conflictos laborales de e i te be en la audiencia nacional sino cuál es la opinión del gobierno y así lo articula

por qué porque las relaciones laborales y ahora es cuando

casanova diría horror otra vez este tema sí porque

de interacciones y consisten en obligaciones derechos y poderes

una realidad compleja sin ninguna duda y a su complejidad

que las envuelven los progresos tecnológicos por ejemplo que no es muy importante en el caso

en cualquier caso las relaciones laborales se sustentan en la actuación conjunta de unos actores principales unos actores principales no solo uno unos cómo las debemos hacer cómo debemos hacer las relaciones laborales para que sean de calidad con una fórmula de cooperación entre los actores entre esos actores en un sentido amplio la fórmula del diálogo social ante los desafíos que hoy plantea este mundo y más en el mundo en el que se mueve

y con el objetivo de conciliar los imperativos de la justicia social que aquí ya

con la competitividad con la competitividad en este caso de etb el desarrollo económico se impone necesariamente el diálogo social diálogo social que es tomar decisiones

inclusión de actores afectados por las mismas porque debe estar fundada en la negociación en la cooperación y el consenso es decir es responsabilidad de todos y de todas esto lo quiero dejar claro porque parece que solo es responsabilidad de la dirección de etb y no aquí todos somos responsables

el ámbito de las relaciones laborales sin ninguna duda señora agirre es muchísimo más amplio que el de juzgar concretos conflictos laborales

qué posición ocupan los conflictos colectivos judicializados en el mundo de las relaciones laborales

que ocupa uno de los últimos por lo menos cronológicamente

de que no ha llegado a desarrollarse adecuadamente las relaciones laborales

la experiencia también nos dice que también son susceptibles de ser corregidos aunque estuviesen o aunque estén en esa situación

para mí perseguir el ámbito vasco de relaciones laborales es una brújula

en materia de trabajo es una brújula también para mi grupo parlamentario acotada esta cuestión creo que tenemos que centrarnos en el núcleo

que los conflictos colectivos de etb se juzguen en los juzgados vascos cuál es el marco normativo que regula esta cuestión la ley reguladora de la jurisdicción social

órganos judiciales para entender en materia de conflicto colectivo al leer la norma al leer estos artículos de la norma queda constatado no hay tampoco que hacer una excesiva

en concreto serán competentes la sala de lo social de los tribunales superiores de justicia en este caso el tribunal superior de justicia del país vasco al

a eso hace referencia al superior de justicia del país vasco así lo entiendo decía que el tribunal superior de justicia será competente cuando el conflicto laboral extienda sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un juzgado de lo social y no superior al de la comunidad autónoma

competente la sala de lo social de la audiencia nacional

a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma es decir esto qué implica que hay que atender a la extensión de los efectos

del conflicto laboral si hay un conflicto colectivo que afecte además de a los centros de bilbao en el caso de etb donostia a iruña y o a madrid y o a barcelona será competente la sala de lo social de la audiencia nacional en función de esta ley

me gusta no no pero es lo que determina la ley

qué me parece la audiencia nacional pues muchas veces he dado mi opinión sobre la audiencia nacional me parece un tribunal excepcional

un anacronismo jurídico y jurisdiccional eso es lo que me parece pero aquí no estamos hablando de esto aquí estamos hablando señora agirre

etb o el gobierno no lleva nada a ningún sitio señora arana no tiene que ver con la decisión de una dirección esto

tiene que ver con la ley reguladora de la jurisdicción social que coloca

algunos concretos conflictos o supuestos allí en la audiencia nacional no todos algunos concretos pero los coloca allí cuando el veintisiete de abril el desarrollo a su pregunta en su segundo turno

decía usted esto es muy simple hoy también nos lo ha comentado así

se resuelve yo estaba expectante cuál será la cuestión decía usted no sabemos por qué etb no hace ese cambio es muy simple

reconduzca la situación cambiando el término nos dice cambiando el término centro de trabajo por el término lugar de trabajo según usted es así de simple a mí de entrada no me parece tan simple

unos comentarios al respecto pero más allá de los comentarios del señor

podemos cambiarle el nombre de centro a lugar incluso nos podemos poner creativos núcleo sitio emplazamiento área sector de trabajo

esta realidad como la llamemos esta realidad va a venir determinada por el artículo uno punto cinco del estatuto de los trabajadores unidad productiva dice

que sea dada de alta como tal ante la autoridad laboral lo relevante es la existencia de cuenta de cotización

es un debate técnico se ponga usted como se ponga es un debate técnico no creo que su solución su simple solución de la que nos hablaba

espero que no apunte usted por ahí a no realizar las correspondientes cotizaciones

se lo pregunto su sencilla solución se refiere a que etb no cumpla con sus obligaciones

yo creo que usted no está planteando esto por eso después de darle muchas vueltas a su planteamiento preparamos nuestra enmienda la idea nos la da usted además

nosotros entendemos que nuestra enmienda es un planteamiento creativo en la línea que usted defiende en su pregunta incluso sacarlo de lo judicial y nos decía el señor andueza también

de lo relacional sin embargo ustedes se han quedado en su planteamiento básico en lo judicial un planteamiento alejado de la realidad

totalmente desenfocado como ya se ha comentado o como ya lo hemos comentado y que me parece realmente sorprendente pero es posible que a mí todavía me sorprenda algo más

va a venir de si nosotros vamos a apoyar la enmienda transaccional se puede ir sorprendiendo ya porque ya le digo desde ahora que sí

que yo también me he sorprendido y bastante con este asunto

yo no me voy a referir ni al ámbito vasco judicial

asunto concreto y a la actuación de e i te be y del partido nacionalista vasco no nos engañemos en este asunto concreto que no es más que una muestra más de la

y de transparencia que tiene la dirección de e i te be porque quiero empezar diciendo que en el consejo de administración de e i te be tuvimos conocimiento de este asunto porque fue explicado por los sindicatos que pidieron explicarlo e hizo falta votar

que los sindicatos pudieran explicar la situación y en un alarde más de esa transparencia y esa capacidad de diálogo

que con que hablara uno suficiente y solo pudo entrar uno a explicar el asunto

del país vasco porque la empresa estaba vulnerando una serie de derechos sindicales en concreto

una gran capacidad de diálogo por parte de la dirección de e i te be y la sorpresa fue

que puso voluntariamente e i te be que por eso existe la sentencia porque e i te be lo alegó es una cuestión de incompetencia porque lo que quería era llevar el asunto a la audiencia nacional no no no

esa cuestión de incompetencia pues a lo mejor el tribunal no se hubiera pronunciado sobre la misma pero fue lo primero que hizo querer llevar voluntariamente la resolución de estos conflictos a la audiencia nacional

diseccionar exhaustivamente la vertiente jurídica porque lo he dicho en muchas ocasiones esta cámara no es un tribunal judicial

desde el punto de vista jurídico como he dicho fue la dirección la que solicitó que este conflicto se cuándo tiene competencia la audiencia nacional

y para conseguir esto a las corresponsalías de madrid y barcelona

centros de trabajo y usted lo ha mencionado el artículo uno punto cinco del estatuto de los trabajadores qué requisitos dice que constituya una unidad productiva

laboral pero este último no es un requisito para nombrarle centro de trabajo los dos primeros son los que son los requisitos y en qué se ha basado la sentencia

corresponsalías de madrid y barcelona son una unidad productiva y que tienen una organización específica y autónoma de verdad de verdad

de verdad el corresponsal de madrid y el corresponsal de barcelona de verdad es una organización específica y autónoma

en su página web distingue entre sedes y corresponsalías si son lo mismo si son todos centros de trabajo por qué no le llama todo igual por qué no le llama todo igual pero no

a una cadena de información sea prensa escrita televisión o radio pero en sí mismo el corresponsal no es una organización propia o autónoma no es de trabajo que es lo que ustedes alegan lo que hacen es recoger noticias y enviarlas al centro de trabajo en bilbao o en miramón

y por eso por eso no excede la competencia de la propia comunidad autónoma

qué es lo que hace y dice la sentencia que da igual que se llame centro de trabajo que lugar de trabajo que es lo mismo no

la idea está en la unidad de producción y jurisprudencialmente y doctrinalmente se distingue porque centro de trabajo es en el ámbito en el que se trabaja coordinadamente en el que hay una organización de trabajo inspirada por un propósito empresarial pero por ejemplo por citarle

la profesora maría josé romero rodenas catedrática de derecho del trabajo de la universidad de castilla la mancha

solo si son autónomas susceptibles de trafico jurídico independiente es decir idóneas para funcionar como empresas diferentes sin cambiar la organización de trabajo con mero cambio subjetivo y decía pueden computarse centros de trabajo en otro caso

son absolutamente distintas con lo cual qué hace e i te be falsear forzar la realidad para ir a la audiencia nacional y llamar centro de trabajo a lo que no lo es a lo que no lo es no sé si lo impide pero desde luego

dificulta la defensa de las trabajadoras y los trabajadores y yo

no no yo a lo que me opongo es al falseamiento de la realidad y de los hechos reales que está haciendo e i te be para ir a la audiencia

es que no lo es a e i te be lo que le interesa es alejar y cuanto más difícil se lo pueda poner a los trabajadores porque se caracteriza por ello

la nuestra porque yo le decía que esto además de la vertiente jurídica tiene una vertiente política y usted ha hecho la referencia y ya se ha puesto la venda antes de que

usted ya lo sabe porque cosas veredes que farán fablar las piedras o dicho de otra manera lo que hay que ver lo que hay que ver

que la sentencia esta sentencia que usted ha aludido es como las tablas de la ley cuando ustedes han cuestionado las sentencias de los tribunales de nuestra comunidad autónoma las de la audiencia nacional las del tribunal supremo las del tribunal constitucional

todo tipo de resoluciones judiciales oiga y esta parecen las tablas de moisés parecen las tablas de moisés que por cierto son

perfectamente la audiencia nacional lo puede revocar y declarar su incompetencia porque considera que no es un centro de trabajo la corresponsabilidad ni de madrid o de barcelona o sea que vamos a ver

no es discutido hay sentencias para todos los gustos y nosotros

como no puede ser de otra manera pero ya le digo es que hay distintos tipos de sentencias sobre este asunto y como digo aquí cuál es la interpretación

a la audiencia nacional y es que lo que le decía lo que hay que ver el partido nacionalista vasco abogando porque la competencia resida en la audiencia nacional

que llama la atención señorías sobremanera esa querencia de e i te be y del partido nacionalista vasco por la audiencia nacional

pedía la supresión de la audiencia nacional en su opinión para juzgar los delitos el juez natural es el más cercano y el más próximo según el parlamentario jeltzale el proyecto del pnv consiste en una justicia lógica eterna y completa en euskadi

y hemos pasado de querer una justicia completa en euskadi

voluntariamente llevar el conflicto a la audiencia nacional en noviembre del año pasado el partido nacionalista vasco por

excepcional que no tiene sentido que debe desaparecer ahora eso sí

menos para llevar los conflictos colectivos de e i te be para ese caso

que es mucho mejor y parafraseando al señor egibar que me va a acabar cobrando copyright buah chaval buah chaval lo que hay que ver

el señor egibar propone en la ponencia de autogobierno ha propuesto

que tiene que haber un compromiso con un poder judicial vasco

y después qué va a hacer va a hacer lo mismo se va a quedar en el baño para no tener que votar en contra de esto de que los

de pedir un poder judicial vasco ahora diga no no

la verdad es que cuando se trata de conseguir un resultado favorable a nuestros intereses

la labor de los sindicatos en defensa de los derechos

forzamos la máquina a la interpretación que se lleve a la audiencia nacional a ver si así

es más favorable como le he dicho cosas veredes que farán
fablar las piedras eskerrik asko llanos anderea

aquí el partido popular dando lecciones de defensa del autogobierno al partido nacionalista vasco

sorprendida y hasta divertida es un gusto a estas horas en este entorno es un lujo

y también sorprendida que aquí con defensores acérrimos del acuerdo y del diálogo y demás no hayamos conseguido llegar a un acuerdo en este punto porque por nuestra parte estábamos totalmente dispuestas a asumir lo que era toda la enmienda a la totalidad lo queríais un poquito más que no está recogido y bueno pues no es esa la mejor disposición para llegar a acuerdos queríamos o hubiéramos recogido todo y hoy ha sido un bonito ejemplo

ese acuerdo ese diálogo social que reclamamos a la dirección y al comité de empresa de etb pues bueno no hubiera estado mal empezar por aquí y también me ha sorprendido un poquito

lo que decía el señor andueza el señor

hay que cumplir la ley en cierta manera no es un poquito desautorizar lo que está haciendo en este momento la dirección de etb que esta misma mañana como ya he comentado se ha reunido con representantes del sindicato lab para llegar a un acuerdo a pesar de esa ley y

aurkitzen uste dut borondatea badago badago bidea egiteko no podemos permitir que ni el sector público ni el privado se estatalicen porque es aquí en ninguna otra parte donde se debe decidir nuestro futuro

a lo que ha venido haciendo la dirección de e i te be hasta la fecha pero es que lo he dicho en mi intervención he dicho que entendemos

no es la adecuada sino todo lo contrario es que hay que cambiarla hay que reorientar el rumbo y que las cuestiones no deben de realizarse ni por imposición ni deben de

solución claro claro que los socialistas vascos hemos hecho una enmienda a la totalidad a ese tipo de prácticas porque entendemos que la vía es otra la vía es

la del consenso la de la participación de los agentes sociales a través de los sindicatos de la participación de los trabajadores y trabajadoras la búsqueda de una solución dialogada a los conflictos la utilización incluso de la mediación si a través de ese diálogo no se consigue algo y como última instancia

a los tribunales por tanto creo que no hemos dicho nada que no hayamos venido diciendo

su réplica y en cuanto a que los servicios públicos se estatalicen no creo

de este tipo ponga en riesgo o vaya encaminada la estatalización de los servicios públicos sino

competencial en el ámbito judicial que está perfectamente definida clara así lo dice la sentencia pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la estatalización de los servicios públicos en este caso

de e i te be por tanto qué quiere que le diga me ha sorprendido un poco

señora llanos doy la bienvenida a la nueva etapa que se ha abierto en el partido popular además lo digo con absoluta sinceridad porque le estaba escuchando aquí en la tribuna y de verdad que

no le reconocía ha habido un momento que no sé si es por sus palabras o por qué que me ha dejado usted

los del partido popular sino pensaría que estaba usted en la bancada del pnv

ustedes desde cuándo han decidido defender un marco propio de relaciones laborales desde cuando lo han decidido me gustaría saberlo porque le he visto muy vehemente en esa cuestión le recuerdo que van a apoyar

lo han puesto encima de la mesa y me parece muy legitimo oiga y que si han cambiado de rumbo en este sentido

en madrid al respecto desde cuándo no respetan una resolución del tribunal superior de justicia del país vasco

claro y definido el ámbito competencial y donde debe de resolverse esta cuestión

reniegan ustedes de que una cuestión de este tipo se dirima en la audiencia nacional desde cuándo en fin me sorprende mucho de verdad creen que e i te be puede tener competencias para decidir

aquí en euskadi o en madrid de verdad lo creen de verdad lo creen

me sorprendería mucho en cualquier caso en relación

de trabajo usted ha mencionado dos premisas y una tercera alegaba que la dirección de e i te be se sujeta o se aferra a la tercera pero es que da la casualidad que se cumple con las dos primeras

que son requisitos indispensables entonces dónde está el problema es que incluso puede darse el caso que un corresponsal un enviado especial pueda estar

siga siendo bilbao y no hay ningún problema pero es que no es este caso es que no es este caso por tanto vamos a ver si empezamos a tener claras algunas cosas pero en fin qué quiere que le diga le he visto muy aferrada a euskadi le he visto muy aferrada a la tierra ongi etorri

pozgarria da yo veo que han superado ciertas cosas y que de alguna manera también en fin ya hay posturas

ha comenzado a realizar la ciaboga ongi etorri

en el que ustedes han superado ciertas cuestiones y ahora que hay que volver a renovar la audiencia nacional espero que en este sentido

y ayuden al nuevo gobierno a poder hacer una audiencia nacional mucho mejor que la que tenemos actualmente eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna aiartza euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

agirre el acuerdo nos hablaba del acuerdo

yo creo que ha estado cerca que hemos estado cerca aunque me ha parecido que cuando usted dice pero querían un poco más no no no queríamos un poco más era simplemente nosotros solo hemos hecho ese planteamiento

y son ustedes los que quizás querían un poco menos o no sé pero en cualquier caso ha habido yo he entendido que ha habido intención de acuerdo y ha habido intención de acercarse el acuerdo entre nosotros

el acuerdo que ustedes toman desautoriza a etb pues yo creo que no porque ustedes toman un acuerdo exclusivamente

un nivel judicial o de conflictos colectivos judicializados

referencia además a todos los conflictos colectivos sino a unos concretos que tengan unas características concretas

y eso desautoriza a que se pueda trabajar a que se pueda acordar en otros ámbitos o incluso en los mismos yo creo que no

o de perseguir acuerdos aun habiendo cuestiones que estén judicializadas e incluso estas cuestiones se pueden corregir lo que le comentaba

en mi primera intervención y luego hay otra cuestión que es el debate técnico un debate técnico a ver el debate que usted plantea es un debate técnico los dos títulos

y plantee un debate más amplio de las relaciones laborales como lo lanza al gobierno en su pregunta pero el debate que usted plantea es un debate técnico y yo me ciño a las reglas del juego que usted plantea

a este órgano jurisdiccional es lo que usted plantea y entonces busco las claves de ese debate técnico sin más señora llanos

que no sé quién es lo de le dijo la sartén al cazo cuando habla de sobreactuación

la sartén o quién es el cazo en este caso pero yo creo que no he sobreactuado aquí si ha sobreactuado alguien es usted

y estamos hablando de un debate técnico y yo no abogo para nada en llevar o a llevar asuntos a la audiencia nacional para nada

ni me he referido a la sentencia y en una concreta apreciación a la audiencia nacional porque yo entiendo que se tenía que haber creado en su día el estado debería haber creado

central de lo social etcétera para hacer ese efecto con el tribunal supremo

supuestos en cualquier caso me parece sigo manteniendo lo que ha dicho la audiencia nacional

estrictamente técnica yo no he hecho referencia tampoco a la sentencia aunque efectivamente me he basado en alguna de sus claves y usted decía

y eso lo dice la ley eso lo dice la sentencia y eso lo dice la ley qué ley dos leyes la ley reguladora de la jurisdicción social

de los trabajadores donde por cierto se recogen algunas cuestiones relacionadas o muchas de las cuestiones relacionadas con la reforma laboral

el dos del quince su estatuto de los trabajadores en referencia

se sustancia que es yo no he dicho tampoco sea igual lugar que centro lo que he dicho es que da igual cómo lo llame usted que lo importante y esa es la clave del debate técnico lo importante

la cuenta de cotización eso es lo importante señora llanos eso no

defendió mejor a una consejera socialista de los propios socialistas y hoy a usted le ha defendido mejor el señor

y de las palabras que yo he dicho anteriormente señor

no se atribuya el monopolio del autogobierno no se atribuyan no sé sorprenda no sé de qué se sorprenden nosotros somos defensores del autogobierno y de la ley y de la aplicación de la ley yo no sé de qué se sorprenden porque yo esas cuestiones las he dicho aquí muchas veces

ni falsee las cosas que ya somos todos muy mayores y yo ya llevo mucho tiempo en política

no no ni tampoco he defendido un poder judicial vasco propio no tampoco tampoco eso es lo que le gustaría a ustedes

para seguir en el sillón que no lo descarto pero nosotros no no

la que tenemos la que tenemos en este momento la que establece cuáles son las cuestiones que se tienen que llevar al tribunal superior de justicia del país vasco y cuáles a la audiencia nacional

pero qué es lo que nosotros consideramos ahora y teniendo en cuenta la cuestión técnica

porque e i te be en la vista y también lo dice la sentencia en los antecedentes de hecho en la vista lo primero que alega es una cuestión de incompetencia y cuando se alega una cuestión de incompetencia a la sentencia lo primero que entra a debatir

de oficio porque es verdad que es una cuestión de orden público y de oficio lo pueden los propios tribunales determinar o no o no

porque e i te be en la vista la primera cuestión que plantea es la incompetencia y que se lleve el asunto a la audiencia nacional y para ello qué es lo que hace

es un centro la corresponsalía de madrid enorme tan enorme que no tiene derecho ni a representantes sindicales con una organización autónoma y propia venga que usted lo que pasa es que se lo he dicho señor aiartza

les da igual es que ustedes la ideología la utilizan la ideología la utilizan para lo que quieren oiga amigo es que si

como es la audiencia nacional me viene mejor pues mira casi mejor me olvido

porque igual la resolución de la audiencia nacional como no pueden ir la defensa de los trabajadores se va dificultar pues entonces igual como la sentencia me viene mejor pues mira pues entonces yo paso olímpicamente de la defensa de los órganos judiciales vascos poder judicial vasco verdad da lo mismo que el señor egibar lo diga en la ponencia de autogobierno

si les viene bien las aplican que eso también tenemos así de ejemplos aquí porque amigo es que como dirían los catalanes la pela es la pela y si yo aquí puedo

y consigo una resolución que me sea favorable y si para eso

se lleva donde dije digo digo diego y y fenomenal y eso es lo que se ha hecho y por qué nosotros vamos a votar a favor

la enmienda porque no habla de tribunales vascos habla de que se asuma el compromiso de residenciar los conflictos colectivos

sino hace fraude de los hechos y considera las corresponsalías de madrid y barcelona como lo que son

y considera que de esa manera los conflictos colectivos solamente se circunscriben a la comunidad autónoma del país vasco y aplicando todas esas leyes que usted ha dicho con las que yo estoy de acuerdo y que yo respeto entonces en ese caso la

para seguir provocando conflictividad laboral como se está haciendo en este momento muchas gracias eskerrik asko llanos anderea eztabaida amaitu denez

gracias señora presidenta señores consejeros señorías

nuevamente la protección de los montes de vitoria vuelve a la agenda pública alavesa es en el año dos mil diez y a instancias de este parlamento cuando

de los recursos naturales del área de los montes de vitoria y atendiendo la ley de conservación de la naturaleza del país vasco el departamento de medio ambiente inició los trabajos técnicos para ir avanzando en su compromiso elaboró un documento previo al plan de ordenación de los recursos naturales de los montes de vitoria donde

en el año dos mil doce mediante orden de la consejera de medio ambiente se acordó la aprobación inicial del plan de ordenación de los recursos naturales del área de montes de vitoria y se inició el periodo de exposición pública

se recibieron sesenta y dos alegaciones en total se acabó la legislatura y esas alegaciones las contestó ya el nuevo gobierno en junio de dos mil trece

tanto las juntas administrativas como los particulares pedían la exclusión de esos terrenos de dicho ámbito

y es en dos mil quince cuando se aprueba definitivamente afecta a un área de

es en esta legislatura y en dos mil quince cuando se rompe la unanimidad que concitaba la figura de parque natural para los montes de vitoria

cuando aparece la controversia había unanimidad en el ayuntamiento de vitoria en las juntas generales de álava y en esta cámara y de la noche a la mañana se rompió en junio de dos mil dieciséis el diez de junio en esta cámara se aprobó la proposición no de ley por el que decíamos el parlamento vasco exige al gobierno vasco que cumpla las decisiones adoptadas en esta cámara y en consecuencia de continuidad a la tramitación

aprobando para ello un plan de ordenación de los recursos naturales que proteja adecuadamente el ámbito definido aprobado inicialmente y despeje todo este espacio de amenazas de transformación

que el departamento de medio ambiente planificación territorial y vivienda de este gobierno tiene voluntad de cumplir los compromisos adquiridos en esta cámara y para ello habla de la búsqueda del mayor consenso social institucional y de particulares así como la búsqueda de la mejor figura de protección ambiental para los montes de vitoria en estos momentos se está revisando los trabajos y actuaciones realizados y valorando la revisión del plan de ordenación

que anteriormente se había aprobado inicialmente la

delimitación propuesta por ese plan

su posible actualización y su posterior integración con la gestión cec con los montes altos de vitoria tal y como ya aprobamos en la ley de la naturaleza que

documento integrando la planificación del espacio y en eso estamos desde el grupo popular estamos intentando recuperar el consenso institucional en el ayuntamiento de vitoria se ha dado ya se consiguió dicho consenso

el proyecto inicial de parque natural tiene una superficie de en torno a trece mil hectáreas de las que doce mil doscientos

y el resto es área perimetral en total afecta a terrenos de siete municipios

y a treinta y tres entidades locales menores pertenecientes a esos municipios el ochenta y cinco por ciento del suelo

los pueblos sus vecinos han visto amenazada la gestión de sus espacios en los montes de vitoria y también sus actividades agrícolas y ganaderas con la llegada de un parque natural que podía afectar a sus cultivos a sus granjas o a sus planeamientos una figura de protección les ha dado vértigo

nosotros iniciativa que planteamos instamos a que en este proceso se incorporen a los agentes implicados que nos parece muy importante

solo desde la transparencia se gana la confianza y eso nos parece muy importante es verdad que hay elementos nuevos en el conocimiento de algunos valores sobresalientes de la de muchos de ellos están fuera

por ejemplo hay sesenta y siete humedales algunos de ellos con especies muy amenazadas como el cangrejo de río o la rana ágil está claro que se requiere de un esfuerzo

sostenible y además buscar la convivencia entre la naturaleza y quien vive en el entorno y para ello hay un trabajo

redactar un nuevo plan de ordenación de los recursos naturales que sea aprobado inicialmente abrirlo a la información pública atender las sugerencias las alegaciones las aportaciones y tratar de determinar su aprobación en esta legislatura casi diez años con el acuerdo inicial con la controversia pero intentando recuperar

un nuevo acuerdo a la iniciativa que nosotros presentamos presentaron algunas enmiendas y hemos llegado a una enmienda de transacción en la que décimos lo siguiente

para el área de montes de vitoria que a través de la figura de protección adecuada

natural de la amenaza de pérdida de valores naturales en el punto dos décimos que instamos al gobierno vasco a incorporar a los agentes sociales e institucionales implicados

el máximo consenso instamos al gobierno vasco a establecer un calendario adecuado con el fin de que este expediente concluya en la actual legislatura vasca

a que junto con la diputación foral de álava se comprometa con el respeto a las competencias de los concejos así como a que se mantengan vigentes los usos y costumbres

han propiciado su buen estado de conservación en el punto

tanto privados como roturos favoreciendo la actividad agrícola y ganadera como forma de vida en un sector importante de la población del ayuntamiento de vitoria gasteiz y del territorio histórico de álava

décimos que el mencionado plan de ordenación de los recursos naturales

lleve a cabo programas de desarrollo socio económico en las poblaciones integradas

periférica de protección previendo los incentivos y las partidas económicas necesarias

este es el acuerdo al que hemos llegado espero que todos los grupos también el grupo no enmendante

recuperar el acuerdo que en su día tuvo es también una petición del departamento porque yo creo que le refuerza en su trabajo y por lo tanto yo animo
a que el grupo no enmendante también apoye esta iniciativa eskerrik asko

le alegra que se recupere el acuerdo en este tema y que se recupere también su impulso y no décimos que sea sencillo pero sí que décimos que es absolutamente necesario y además también creemos que es necesario ampliar los consensos conscientes de todo eso euskal herria bildu junto con los grupos que forma elkarrekin podemos introdujimos en los presupuestos del ayuntamiento de dos mil dieciséis una partida para realizar

aunque también hay que decir que la partida nunca se desarrolló la verdad es que empieza a ser una costumbre

pero el acuerdo de hoy y el impulso es necesario y es importante sabemos que no va a ser fácil también por los precedentes que hay en la zona por ejemplo el caso de izki y este debe de ser un ejemplo para trabajar de otra manera

también son conocidas y esperamos que se usen otras experiencias de éxito de trabajo conjunto

hemos insistido desde euskal herria bildu en la financiación necesaria para pasar de las palabras a los hechos creemos que hay que recoger los compromisos de financiación para que el plan rector contemple también el desarrollo socioeconómico de los municipios afectados en el ámbito territorial del espacio protegido creemos que ese el mensaje que hay que trasladar a esos municipios y a esas comunidades

de protección la definición también de qué zonas deben de ser espacio protegido y cuales zonas periféricas

y nos parece muy importante a los entes locales a los municipios y a los concejos hay que incorporar también a la representación del primer sector hay que garantizar el máximo nivel de protección ambiental

como decía la señora lópez de ocariz ya no sabemos en cuentas veces hemos tratado el tema de los montes de vitoria en el parlamento

y es verdad que ahora ya está en una fase avanzada y que la posibilidad de un acuerdo más amplio hoy parece que va a ser una realidad porque al menos cuatro de los cinco grupos hemos firmado la enmienda el pasado mes de abril también se debatió en el ayuntamiento de vitoria y esta vez esa iniciativa contó con la unanimidad de los allí presentes es verdad que es un tema que viene de muy lejos que ha sufrido cambios y modificaciones a lo largo del tiempo

incluso me atrevería a decir que los montes de vitoria en un momento dado fueron un daño colateral y otro tema polémico y muy controvertido de ahí la cronificación y el planteamiento del perímetro concreto que además se trabajó en este parlamento

blindarla y evitar que en esa parte del territorio se pudieran desarrollar unas actividades concretas que contaban con el posicionamiento en contra de mucha parte de la sociedad

este tema comienza como todos sabemos en la diputación foral de álava en el año dos mil nueve

eólicos y la posible explotación del fracking que yo creo que fue lo que determinó como digo

por bosques de los montes de vitoria y pastizales y espacios agrícolas colindantes

así como treinta y tres entidades locales menores pertenecientes a esos municipios

durante esos años y a partir de esta paralización en el parlamento hemos debatido

en forma de proposiciones no de ley de mociones de interpelaciones porque creo que aquí

y es ahí donde entra la consejera unzalu a trabajar en su departamento en el año dos mil dieciséis se exige el cumplimiento de las decisiones adoptadas por este parlamento en el ámbito de los montes de vitoria se incluye también el lic de los montes altos de vitoria el cual abarca una amplia superficie

también es importante decir que el ayuntamiento representa el sesenta y siete por ciento de la delimitación planteada se reciben alegaciones se tienen en cuenta se sigue trabajando en el expediente final

al mismo tiempo se estaba tratando la tramitación de los espacios lic de la red natura dos mil europea

en que la tipología de los espacios naturales protegidos quedan definidos como parque natural biotopo protegido árbol singular y los espacios

y lo que queda claro es que se trata de superficies muy distintas dependiendo de la figura de protección final

asimismo se han producido avances en el conocimiento de algunos valores ambientales de la sierra

algunos de ellos con especies muy amenazadas o varias poblaciones de flora en grave estado de amenaza en la comparecencia de la señora viceconsejera elena moreno ya nos informó que en diagnóstico realizado por el departamento en el área de montes de vitoria se presenta un potencial natural

en el artículo diez de la ley de conservación de la naturaleza del país vasco a estas alturas del debate parece que ya estamos todos de acuerdo en que es importante que se logre la máxima protección del espacio de montes de vitoria y eso se logra con un porn adecuado a esos fines y adaptado al territorio independientemente de la figura de protección que se elija finalmente

qué nos puede aportar cada una de las figuras de protección que yo creo que es donde estamos ahora y donde está el gobierno

olvidar el respeto competencial en euskadi la gestión de los espacios naturales de protección corresponde a las diputaciones es importante que la decisión última cuente con el mayor acuerdo posible y que surja tal y como se dijo en la comisión de una comisión interinstitucional compuesta por el gobierno la diputación el ayuntamiento y los ayuntamientos afectados

durante muchos años y es verdad que siempre hemos tenido una predilección por una figura de protección más que por otra

nos ocupamos en negociar las iniciativas entendemos la importancia que tiene la delimitación del área que establezca también una zona perimétrica de protección apostamos por trabajar en la búsqueda del mayor acuerdo posible

entendemos que la enmienda firmada recoge las sensibilidades de los diferentes grupos parlamentarios hay que esperar a que el departamento del señor arriola termine el expediente y veamos cuál es la figura de protección más adecuada que se nos ofrece con informes técnicos y a partir de ahora seguir apostando por que los montes de vitoria

que la naturaleza no necesita de la felicidad y en euskadi en mil novecientos ochenta y nueve

en base a la legislación estatal y sin un plan de ordenación de los recursos previo lo que es verdad provocó serios problemas de gestión los parques ya

y la ley de conservación de la naturaleza posterior que se aprobó en junio del noventa y cuatro ya exigía obligatoriamente que antes de la declaración de un espacio o de cualquier figura

ese plan de ordenación de los recursos ese plan consiste según la ley en un análisis del estado de conservación de los recursos la determinación de las posibles limitaciones de usos

de uno de los regímenes de protección que establecía la propia ley que entonces eran parque natural o biotopo protegido hasta que llegó la normativa europea a través de la apuesta en marcha de la red natura dos mil que establece mecanismos de protección de especies y espacios singulares que entienden son escasos en la globalidad de la ue

de que lo que en algún lugar llega a ser prácticamente una plaga al ser el único espacio de la unión europea que lo contiene resulta que está en peligro de extinción

tanto en sus vertientes desarrollista o proteccionista no deja de ser un permanente interventor en el equilibrio dinámico de la naturaleza decidiendo lo que se debe hacer siempre con el ánimo de arrimar el ascua a su sardina

explica sin dudar la inagotabilidad de la naturaleza y en el otro la necesidad de restaurar equilibrios perdidos decidiendo además cuáles son esos equilibrios

o bien el bienestar socioeconómico o bien para el bienestar

algunos le llaman ecocapitalismo y ecosocialismo

centro de toma de decisión sobre el resto del mundo vivo y mientras pensaba esto montes de vitoria se señaló dentro del nuevo concepto de red natura dos mil como lugar de importancia comunitaria el año dos mil tres declaración que siguió su tramitación a lo largo del tiempo y mientras seguía pensando en todo eso empezó otro proceso que nos trae al asunto que aún tratamos que no es otro

de montes de vitoria que no el parque natural de montes de vitoria

al demandarse desde el ayuntamiento de gasteiz tal declaración al gobierno vasco cuando lo que había que demandar era un estudio y un plan de ordenación como señala la ley para que ese plan establezca si merece que se declare como espacio protegido y luego establezca qué figura se debe utilizar

hacer al antropocentrismo euskadi es por un lado un espacio físico

pero su densidad de estudiosos y científicos de la naturaleza por metro cuadrado es elevadísimo y desde los primeros años setenta del pasado siglo se observa un continuo de espacios señalados a proteger un catálogo iterativo que se fue utilizando en la sucesiva declaración de espacios

señalándose expresamente aquellos lugares no determinados en el listado deberían ser aprobados

aunque no dudo que tienen valores naturales francamente interesantes no aparecieron jamás

aquella demanda de parques naturales sin análisis previos conllevaba otro error conceptual el exigirlo para protegerse de potenciales desastres

no deseable hacia la zona de montes de vitoria y está muy bien

pero es que no lo desee el ayuntamiento que en su mano tiene el instrumento más potente para evitarlo que es el plan general de ordenación urbana pues carece de sentido salvo que le permitiera solventar las presiones de crecimiento urbano

hacia quien había declarado aquel espacio como parque natural cuando se trata de que en las tormentas cada administración aguante su vela

conservarla preservarla y protegerla y otra cosa es la normativa preventiva que es más de otras áreas de política ambiental y si me apuran de política de defensa el año dos mil diez al hilo de la solicitud municipal gasteiztarra se da la orden

sin prejuzgar su conclusión al tiempo que urgidos por la ue avanzar en la declaración

una parte de la zona se incluyó en los estudios previos para la futura declaración como zec ese mismo año se modificó la ley de conservación de la naturaleza

las figuras de la red natura dos mil luego en conclusión a partir de ese momento

podía elegir una enorme gama de figuras de protección de cada espacio

por exigencias del calendario de la ue se produce la definitiva aprobación

su inmediata inclusión en la red de espacios naturales de euskadi dos caminos de conservación no coordinados uno terminó en decreto mientras el otro sigue inacabado

no fue el mejor de todos porque se puso el carro delante de los bueyes y se exigió una conclusión antes que nada y eso es una perversión de la propia ley al tiempo que tuvo

a pesar de los caminos divergentes hoy en día existen normas y mecanismos que ya están protegiendo lo más

que se comenzó debe finalizarse con las conclusiones que se estimen más oportunas desde el punto de vista técnico y eso es lo que le pedimos al gobierno con la transacción pactada

y algo que consideramos fundamental contar con la gente afectada por tal declaración darle trámite a la audiencia hacer esfuerzos para llegar a acuerdos con ellos así como

efectuada por eh bildu que no deja de ser por cierto una demanda de la propia ley de conservación de la naturaleza que no es otra que definir la financiación

sin ningún daño económico a quienes trabajan en aquel entorno aquella ley del noventa y cuatro que ha tenido varias modificaciones sigue manteniendo un concepto incluido en su origen que indica que los espacios naturales protegidos tienen como objetivos además de varios aspectos con la lógica de conservación uno

contribuya al progreso de las poblaciones y comunidades locales del espacio y su entorno sirviendo como elemento dinamizador

digo esto porque aquella ley actualmente vigente habla de conservar pero habla también de desarrollo rural

multifuncional de la conservación de la naturaleza que entendía que el conservar y proteger no puede alejarse de continuar manteniendo la presencia humana en el territorio así como su actividad económica actividad que por cierto ha sido la que ha mantenido los diferentes espacios en su estado de conservación suficiente para que científicos y administraciones se fijen en ellos y establezcan mecanismos de protección los espacios naturales protegidos no son reservas de la naturaleza en exclusiva no son espacios de convivencia

ríos y seres humanos con actividades económicas por ello si los que viven y trabajan en una zona van a ver modificada la normativa que regula el ámbito en el que viven y trabajan hombre pues parece lógico que sean tenidas

demasiadas veces se ha efectuado la normativa conservacionista del medio rural desde criterios urbanos o ultra científicos demasiadas veces se ha circunscrito la conservación de la naturaleza rural a crear espacios exclusivamente diseñados para el disfrute

y esa no es la manera en la que nuestro grupo quiere que se hagan estas cosas y voy a terminar con una cita de quien yo

que dijo en su trabajo titulado entre la termodinámica y el juego reflexionó pensar que el hombre

ha de estimular la acción cooperativa pero lo importante es mantener una actitud abierta procurando esquivar las presiones momentáneas de las ideologías de moda en realidad las ideologías más militantes se sitúan un poco al margen de la consideración ecológica porque tienen a ver al hombre como algo muy aparte de la naturaleza con el destino

y ahora hablo yo en mi humildad creo y sin haber hablado seriamente con ella que la naturaleza como dijo no quiere la felicidad

consenso e impulso político esos eran desde nuestro punto de vista las dos herramientas fundamentales que pusimos de manifiesto en la comparecencia que solicitamos de la viceconsejera de medio ambiente el pasado mes de marzo para ver cómo desbloquear la cuestión esta de los montes de vitoria consenso e impulso político consenso para compatibilizar la protección de los espacios más frágiles con los usos tradicionales de la población y aquí tengo que desdecir al señor tellería que dice que

y yo creo que los científicos ya han establecido desde hace tiempo que esos valores naturales y no solo los naturales sino también los culturales existen en los montes de vitoria y que por eso precisamente por eso lo que tenemos que buscar es que los usos tradicionales que no todos ellos son sostenibles que esos usos tradicionales sean compatibles con la conservación de esos espacios más frágiles y de esos valores naturales y para eso y en eso sí coincido con el señor tellería

ordenar las actividades humanas haciendo una propuesta inicial estableciendo las alegaciones que sean oportunas y

y eso intentó hacer el gobierno vasco en dos mil diez y sin embargo no se consiguió y entre los factores que propiciaron que no se consiguiera la viceconsejera en su comparecencia dijo tres

de los habitantes la desinformación de los habitantes y también la presencia de presiones externas presiones externas que evidentemente

por eso aunque en este proceso ha habido impulso político también hay que decir que el impulso político con sí mismo no basta necesita del consenso que también he manifestado porque impulso político ha habido impulso político ha habido desde el gobierno lo hubo en dos mil diez cuando se puso en marcha el primer porn y parece ser que lo va a haber en dos mil dieciocho

y también ha habido impulso político desde la oposición porque tengo que recordar que en el ayuntamiento hubo mociones en septiembre de dos mil quince y las ha habido en mayo de dos mil dieciocho

y en este propio parlamento vasco en junio de dos mil diez en marzo de dos mil quince y en junio de dos mil dieciséis pero sin embargo ese impulso político no ha servido de nada sin el necesario consenso por eso cuando desde elkarrekin podemos vimos la propuesta que se hacía por parte del grupo popular

nos pareció que era una propuesta muy adecuada y decidimos no enmendarla no enmendarla porque era una propuesta muy similar a la que había confitado al unanimidad en el ayuntamiento apenas un mes antes

pues una vez más una iniciativa loable de la señora lópez de ocariz sin embargo cuando llega la hora de consensuarla y de transaccionarla

en una transacción como la que tenemos que ni de lejos es la buena propuesta que había hecho ella inicialmente y

y la próxima vez ya le buscaré alguna falta ortográfica algún acento alguna coma que enmendarle para no tener que luego decidir si susto o muerte porque

lo que han transaccionado ustedes que también tengo que decir que en aras de este consenso que vengo defendiendo voy a votar a favor vamos a votar nuestro grupo a favor sí

en primer lugar porque no recoge una figura jurídica clara que era el parque natural de montes de vitoria que sí recogía la propuesta inicial del partido popular

concreta el ámbito de la protección la señora lópez de ocariz pedía que se protegiera adecuadamente el ámbito definido inicialmente

y aquí ahora ya se habla del esfuerzo por ampliar la actual zona protegida que como tenemos que recordar solo es de dos mil hectáreas es decir la diferencia es

y por último también se devalúa bastante el alcance de la protección porque la señora lópez de ocariz en su propuesta inicial hablaba de hacer frente y despejar las amenazas de transformación y de pérdida de valores naturales

cuando realmente ya lo ha dicho también la señora rojo lo que motivó inicialmente en dos mil diez

a la cuestión del fracking y a otras diferentes aun así tengo que decir que en aras a ese consenso que defendemos sí vamos a votar a favor de esta transacción y lo único que espero es que no haya una instancia superior a la que acudir

hasta más allá nos acabemos quedando en que no necesitamos nada y que estamos bien como estábamos que es un poco lo que ha venido a decir el señor tellería en representación del pnv
y por mi parte nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

lo siento por los que me pedían que fuera breve pero es que el señor becerra

número uno hablaba de parque natural y lo hice a propósito porque es lo que hemos defendido siempre pero ustedes ustedes podemos

en la iniciativa que presentaron no han hablado del espacio no dice así

y a la reactivación del proceso anunciado por el gobierno vasco punto

más exigente que lo que hemos aprobado aquí no yo puse esa figura sabiendo que iba a ser corregida porque lo que se está promoviendo desde el gobierno igual que aquí

espacio natural protegido sin determinar la figura que la figura

qué va a acarrear cada figura y eso también va a estar en información pública eso también se va a conocer por lo tanto no me haga trampa no es más exigente lo que ustedes presentan en el ayuntamiento es mucho más bajo mucho más inferior

que vive en el entorno de la agricultura de la ganadería de los ciudadanos de la participación interinstitucional de la participación de los agentes sociales no se han acordado de eso señor becerra por lo tanto creo que

reconoce la solidaridad expresada y demostrada por la sociedad vasca en consonancia reafirma su compromiso con los derechos humanos de todas la personas y en especial

de las personas desplazadas migrantes forzosas solicitantes de refugio y refugiadas

a su alcance en su ámbito de competencia para que el ejercicio de todos los derechos que se les asistan sean real y efectivo lau el parlamento vasco asume en el marco de sus competencias el compromiso de impulsar

las personas residentes o que transitan por euskadi y promover políticas autonómicas y locales que pongan en el centro las necesidades de las personas la convivencia y cohesión social basadas en el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación